arratsalde on denoi en junio pasado vivimos una importante tormenta mediática y política a raíz de la salida a bolsa de la empresa euskaltel y de ciertos elementos que rodearon a está salida en torno a esta polémica había dos elementos que se ponían en cuestión por un lado la propia salida a bolsa el hecho en sí de que se sacara a bolsa una empresa

de naturaleza pública y por otro lado una cuestión que quizás sea más importante pero que fue a la postre la que alcanzó mayor relevancia

por capitanear este proceso de privatización

a favor de uno y en contra del otro o a favor de los dos nuestro grupo eh bildu rechaza tanto la salida a bolsa

hay otros grupos que al parecer están a favor de los mismos ya que en torno a esta cuestión no tienen crítica que hacer

ni al escandaloso bonus cobrado por los directivos

ese proceso vamos a dar una serie de datos porque nosotros en nuestra moción pedíamos que se reprobará la actitud de los equipos directivos de euskaltel y de ciertos responsables y creemos que esa reprobación ese rechazo a la actitud se funda

de rechazables y que tienen una inusitada gravedad y que es responsabilidad de esta cámara en tanto que representantes de la ciudadanía de este país

que aquí ha sido dañado por un grupo de personas que han actuado

y ese bien común euskaltel es una empresa de origen público

en su función y su modelo de empresa que se crea a mediados de los años noventa con el objetivo de que la comunidad autónoma vasca tuviera una empresa propia con presencia en el sector que ya se adivinaba en ese momento

episodios sustanciales pero voy a comenzar digamos la narración de los hechos por tener relación con el tema que nos ocupa de la salida a bolsa a partir de agosto de dos mil doce

que está en propiedad pública como las acciones de esta empresa euskaltel

meses más tarde se materializa estas acciones y la de otros propietarios y

el fondo internacional cable que a su vez representa a otros inversores privados esos fondos a raíz de su entrada en la empresa con un cuarenta y ocho por ciento colocan a su equipo

y empiezan a desarrollar una serie de prácticas que a nuestro entender son las que llevan a la presentación de esta moción

y de la propia empresa y de la mayoría social del país creemos que este grupo internacional cable entra en euskaltel con una intención muy clara

y embolsarse con ello la mayor plusvalía posible a costa de lo que sea a costa del empleo de las relaciones laborales de la inversión tecnológica

para eso para eso se establece un plan de bonos para estos directivos para que actúen como auténticos juramentados de sacar la empresa a bolsa al mayor precio posible soslayando cualquier otro tipo de consideración al lema implícito de todo por la pasta este equipo directivo comienza a desarrollar una serie prácticas empresariales absolutamente

las principales de las cuales vamos a exponer a continuación en euskaltel se impone una estrategia premeditada de destrucción de empleo esto es gravísimo

a raíz de bueno de la transaccional que ha firmado el partido socialista y el partido nacionalista vasco hoy va a quedar sin reprobación hoy va a ser aplaudido

esta destrucción premeditada de empleo que es evidentemente un requisito para la salida a bolsa que hoy estos partidos van a aplaudir se destruye empleo porque al mercado

le gusta las empresas con la menor carga de empleo posible

o porque hay problemas financieros sino que se destruye el empleo de forma premeditada para que la empresa tenga mayor valor para su próxima salida a bolsa

la plantilla pasa de quinientos cincuenta y dos trabajadores a trescientos de los cuales setenta empleos son liquidados y ciento ochenta son externalizados es decir traspasadas sus funciones

la destrucción de estos setenta puestos de trabajo se realiza mediante bajas incentivadas

fundamentalmente como decía setenta empleos destruidos y ciento ochenta externalizados esta es la gestión destinada de la salida a bolsa que hoy algunos grupos van a aplaudir

incluso en los años más duros de la crisis entre dos mil ocho y dos mil catorce

el coste de la plantilla del total incluso antes de iniciar este proceso

era de apenas treinta y cuatro millónes al año es decir menos que los cuarenta y ocho millónes y pico que estamos hablando de bonos el coste de la plantilla no era un coste inasumible no ponía en riesgo nada no era una plantilla desmesurada no había ninguna necesidad

que llevara a reducir plantilla se reduce plantilla y se destruye empleo para que la empresa sea más atractiva en su salida a bolsa y para que los directivos puedan cobrar el bonus establecido mientras tanto se desarrollan otras prácticas antilaborales dentro de la empresa como la congelación laboral y ya décimos

afecta solo a la plantilla de a pie mientras que en el equipo de alta dirección esos salarios

incrementados porque ellos lo valen y la plantilla por lo visto no

y se aplauden y no pasa nada no se señala a los empresarios

las externalizaciones que ha desarrollado la empresa euskaltel también es una segunda vía de reducción de plantilla pero tienen además otro inconveniente añadido que es que se ha descapitalizado

los servicios que tenían una mayor carga tecnológica se ha trasvasado a sendas multinacionales tanto los sistemas informáticos como las operaciones

dejando a euskaltel como una empresa sin elementos tecnológicos punteros que se encarga fundamentalmente

en fin cuestiones menores desde un punto de vista tecnológico y que desvirtúan digamos por esta empresa como puntal de la investigación y de la innovación en este país esta descapitalización tecnológica fue dirigida ni más ni menos por la persona que

la agencia vasca de la innovación y por eso nosotros en nuestra moción pedimos

y se considere que esta persona no está legitimada por haber descapitalizado tecnológicamente a su empresa para ser referente de una entidad de una agencia vasca

y el desarrollo tecnológico del país igualmente se ha a las subcontratas y se ha empeorado la relación con las contratas que trabajaban para la empresa euskaltel se ha presionado a la red de distribución y a la red de tiendas para ajustar los márgenes

de beneficio generando una situación de tensión un clima enrarecido entre la empresa y sus colaboradores y además

del país con una visión cortoplacista han sido sustituidas en sus servicios por contratas de fuera de euskal herria cuando todo este proceso está ya maduro cuando se ha destruido empleo cuando se han externalizado servicios cuando se han apretado y ajustado los márgenes

de sacar la empresa a bolsa y hacer caja los fondos compran a tres y venden a doce ganan cientos de millónes también se puede dar

a tres euros la acción lo que luego valía a doce también hay se ve un poco la visión de futuro

pero es cierto que estos fondos en un cortísimo plazo de tiempo logran unas plusvalías

millónes de euros a cambio de nada a cambio de una inversión que ya digo dura poco y que no aporta a la empresa salvo esa liquidez inmediata que tampoco era imprescindible no aporta nada porque no llegan como socios comerciales

que está en el sector de las comunicaciones a aportar un trabajo conjunto sino llegan como fondos buscan la rentabilidad a corto plazo y como veíamos aunque para ello tengan que apretar al máximo a la empresa a sus trabajadores y a sus colaboradores

y también está el asunto del bonus por supuesto que es el que más se ha hablado esos cuarenta y cinco millónes es el botín que se llevan las personas del equipo directivo que han llevado a cabo toda esta

de especulación que creemos que es necesario rechazar hoy aquí también hay una ultima cuestión de la gestión que nos parece absolutamente escandalosa y es el dividendo extraordinario que antes de salir a bolsa se reparten los principales accionistas un dividendo doscientos millónes de euros que proviene de un crédito

para repartírselo entre los principales accionistas es decir

esa fabulosa cantidad que cualquier empresa vasca se daría con un canto

ese dinero no se reinvierte en nada que tenga que ver con la mejora de la actividad productiva o empresarial

se reparte entre los accionistas como botín porque la empresa tenia margen de endeudamiento

por tanto nos encontramos con una prometida destrucción de empleo con una pérdida de estabilidad y calidad de empleo que se mantiene

con una subida de sueldos de la cúpula directiva paralela a congelación de los salarios de los empleados con una descapitalización tecnológica

con un ahogamiento de la red de distribución y con un lucro indecente

gertatutako guztia esta moción que nosotros hemos presentado no es una moción contra euskaltel es una moción a favor de euskaltel a favor de su prestigio de su dignidad y del modelo empresarial que le ha llevado a ser

euskaltel no está donde está porque se haya gestionado espectacularmente bien

nos gustaría que siguiera estando con unas prácticas evidentemente distintas y más acordes con el modelo original

como una empresa distinta como una empresa que tenía un valor añadido un je ne sais quoi o je suis sais quoi que la hacía distinta

y se va a convertir en una empresa que funcione con esa misma lógica de mercado

esos orígenes esos principios fundacionales en esta empresa pero la bolsa tiene sus reglas y los que vais a avalar la salida a bolsa de empresas que eran públicas aceptáis esas reglas aceptáis las reglas del beneficio a corto plazo

el accionariado y por tanto a la hora de la toma de decisiones entren los especuladores los fondos buitres los tiburones de wall street

vais a aceptar que una empresa que surgió con dinero y esfuerzo público con unos objetivos que iban más allá del puro lucro

pase a ser una empresa normal cotizar en bolsa y además eleváis esta actitud a modelo a seguir pues la verdad

de hoy euskaltel ya ha vendido en bolsa una parte de su capital y se ha podido reconducir la situación del bonus de los directivos por la presión política y social que tuvo lugar

reinvirtiéndose todos los incentivos en acciones y por tanto la situación para analizar la cuestión tres meses después de aquel momento convulso es mucho más serena y nos permite hacer un análisis más pausado del modelo empresarial vasco la posición que los socialistas defendemos en este debate se halla en correspondencia con lo que son nuestras señas políticas de identidad

que además de arraigada en el territorio se comprometa con la sociedad que la creó compatibilizando

con la creación de empleo y el crecimiento económico del territorio la compra hace dos días por parte de euskaltel

supone además de un hito para euskaltel un importante paso de consolidación de la propia empresa en el mercado de las telecomunicaciones de españa

para competir en un mercado exigente como operador líder en el norte del estado y de relevancia en el mercado español y europeo

su fuerte posición y compromiso tanto en galicia como en el país vasco a veces las cosas cobran tales dimensiones que nos pueden hacer perder las referencias

para proceder a la venta de acciones de euskaltel y la infraestructura de fibra óptica en el año dos mil doce

nos parecía que aquella operación era oportuna y estaba justificada tres años después el anuncio del cobro de incentivos en cantidades desmesuradas por los directivos de euskaltel

porque no se reconoce por la empresa valores y compromisos éticos que creíamos instalados en el modelo empresarial vasco y si bien se puede entender que una empresa ni puede ni debe desaprovechar las oportunidades de crecimiento y avance que el mercado le ofrezca creemos desde el grupo socialista que hay una serie de valores y principios

en aquellas empresas en las que para su nacimiento y desarrollo se ha contado con un importante porcentaje de capital público con dinero en definitiva de toda la ciudadanía vasca por eso nos sorprendió y enfadó en el mes de junio la falta de sensibilidad de la dirección de euskaltel

cuando cegada por la cantidad millónaria de los bonus racanearon la inversión de los incentivos en acciones de la empresa se pasó del cero al cincuenta por ciento para al día siguiente posteriormente y tras innumerables presiones políticas llegar al cien por ciento de la inversión en acciones de la propia empresa

y olvidaron lo que supone para la economía vasca un incremento de inversión en esas cantidades millónarias para una empresa

y es por eso que los socialistas hemos planteado una enmienda que luego se ha recogido en una transaccional y que expone tres claves fundamentales de nuestro modelo de ver el tema de euskaltel por un lado consideramos que las prácticas de gestión empresariales

con la búsqueda de la mejora de la competitividad de las empresas pero también con la construcción de un modelo de sociedad más igualitaria más justa en términos sociales y en términos económicos en segundo lugar los socialistas pensamos que la empresa euskaltel

tienen un compromiso con la sociedad vasca por el apoyo concedido con patrimonio público a ese nacimiento de euskaltel y a su desarrollo como un proyecto empresarial estratégico

que euskaltel en sus decisiones estratégicas debe mantener la vinculación de la compañía con euskadi y que ese compromiso con la sociedad vasca debe traducirse en creación de empleo

en la innovación en tercer lugar los socialistas también consideramos que la empresa euskaltel ha de establecer un clima y unas condiciones laborales de calidad en su organización acorde con la disponibilidad de recursos económicos que está más que demostrada con la autorización que otorgó el parlamento vasco en agosto de dos mil doce se daba cumplimiento a la consolidación del marco armonizado de libre competencia

que se había alcanzado por todos los estados miembros de la unión europea

no solo se dotó al sector público de infraestructuras adecuadas de telecomunicaciones mediante su construcción sino que además aportó al mercado la infraestructura que tenía disponible

a euskaltel y esto permitió que la competencia entre operadores de los diversos servicios de telecomunicaciones fuese aquí en euskadi una competencia efectiva y además real

el gobierno vasco contribuyó a que euskaltel fuera el segundo operador de telecomunicaciones en el año dos mil doce en la memoria justificativa que avalaba aquella

se decía textualmente el mercado vasco de las telecomunicaciones se ha ya liberalizado y es el momento de actuar y cumplir con el papel que le corresponde a la administración en el sector

de hacer valer el principio recto recogido en normativa que era el denominado principio de intervención mínima de la administración

a las diferentes modalidades en que una administración puede estar presente en un operador de telecomunicaciones los socialistas vascos en la pasada legislatura

especialmente sectores estratégicos y en sectores emergentes como uno de los elementos importantes y claves para la salida de la crisis económica además los socialistas creamos entonces los planes compite el plan lidera

de la competitividad que decidían abordar y potenciando proyectos de país estratégicos

proyectos emblemáticos como apuestas de futuro con un importante impacto tecnológico e innovador para empresas especialmente con una fuerte implicación para el tejido productivo los socialistas creemos por eso

la salida a bolsa también de la empresa euskaltel por las oportunidades que implica para esta empresa el reforzamiento de sus liderazgo en el sector de las telecomunicaciones

a más fuentes de financiación y porque se favorece su crecimiento y desarrollo futuros pero esto esto no puede hacernos olvidar las obligaciones sociales exigibles a una empresa que como euskaltel tuvo como digo desde su origen un impulso y un respaldo claro de la sociedad vasca

de sus instituciones con patrimonio público en la enmienda que hemos presentado también instamos al gobierno vasco a continuar creando nuevas empresas especialmente en sectores estratégicos y emergentes con la participación y asunción

porque los socialistas pensamos que lo acontecido con euskaltel no debe volver a ocurrir pero también pensamos que lo ocurrido no puede convertirse ahora en la inacción por parte del gobierno vasco para participar de empresas y promover empresas en sectores estratégicos

sabemos que lo ocurrido ha sido lícito que ha sido legal y que el cobro de incentivos es una práctica habitual cuando una empresa sale a bolsa pero la acontecido con los famosos bonus que por su desmesura han llegado a causar

político e institucional que además los socialistas compartimos fue un espectáculo lamentable que no debe volver a ocurrir en circunstancias similares en su momento hicimos público un comunicado en el que considerábamos que aquel anuncio de cobros de incentivos era muy poco edificante para la sociedad vasca

muy alejadas de las economías domésticas de la inmensa mayoría de los particulares sin olvidar el riesgo asumido por los directivos con sus inversiones en euskaltel y lo más o menos habitual que puedan resultar estas prácticas los socialistas vascos pedíamos a los beneficiados por esos incentivos una especial sensibilidad

de forma que la ciudadanía pudiera entender que estos incentivos podían convertirse en inversiones que a su vez se tradujeran en empleo en innovación

si se reinvertían en la propia empresa como así ha sucedido los socialistas esperamos que con la enmienda que hemos transado no vuelva a producirse una situación

como la que ocurrió con euskaltel hace más de tres meses en el mes de junio gracias eskerrik asko corcuera andrea eusko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

demasiadas veces se presentan mociones interpelaciones o proposiciones con un texto conclusivo que descontextualizado de la historia

y mostrando en exclusiva una conclusión simulan que confunde que busca confundir conscientemente la salida a bolsa de euskaltel analizada así en frío con ese único hecho

con todos sus ingredientes con todos sus antecedentes a principios de los años noventa del siglo pasado se dieron los primeros pasos desde el gobierno vasco

fundamentalmente en las tres capitales de euskadi fue una inversión pública

estratégico y en el que en euskadi al menos aún no había

para tanta nueva tecnología en mil novecientos noventa y siete el entonces vicelehendakari ibarretxe y no se preocupen lo cito solo como vicelehendakari explicó en esta misma sede como a lo largo de los años noventa y siete y noventa y ocho

iba a ser arrendada a euskaltel empresa inicialmente configurada entre el gobierno vasco y las cajas de ahorro vascas para lograr ser el segundo operador de telefonía

al tiempo que se fue transfiriendo el personal y demás recursos de la empresa originaria

con el tiempo debería de reducirse drásticamente hasta convertirse como mucho en testimonial

y ya considerado estratégico así como que en la medida en que la empresa auspiciada fuera consolidándose deberían darse pasos para su transferencia al sector privado

nadie se opuso y este ha sido el proceso que durante más de veinte años se ha venido siguiendo para empezar por tanto no parece muy justo ni siquiera razonable

cuando el proceso se ha producido es cierto que ningún grupo cuestionó de una manera contundente al menos ni los primeros pasos ni los que le sucedieron incluida la paulatina venta de acciones del gobierno vasco solo se produjo una oposición

el anterior gobierno trajo a esta cámara la propuesta de venta de las acciones que le quedaban así como

ahora en el último paso del proceso cuando y esto ya es muy importante ya no participa en la administración nos encontramos con la salida a bolsa de euskaltel

líder en banda ancha ultrarrápida televisión digital telefonía

y siendo el operador que más crece en el sector no queda duda de que es una empresa de referencia en el sector y en todo momento se ha mostrado como empresa arraigada en nuestra sociedad

en los que invierte una media de cincuenta millónes de euros anuales y si abandona a unos se acerca a otros por todo eso no entendemos a qué viene tanto enfado salvo que sea un enfado especulativo le voy a dar unos datos euskaltel da cobertura al ochenta y cinco por ciento del territorio de fibra óptica

ha aportado históricamente cerca de mil millónes de euros a las haciendas vascas

sin olvidar que ejerce de empresa tractora tanto en el sector de las telecomunicaciones en euskadi como en otros sectores le parece números que justifiquen estar enfadados con euskaltel no cree usted que precisamente el impulso inicial de la administración seguido del empuje del sector privado

parece que a pesar de todo sí fundamentalmente por su salida a bolsa salir a bolsa que no lo dude tiene que ver con la necesidad de cualquier operador de un determinado tamaño en el sector de las telecomunicaciones que quiera mantenerse en el mercado actual

y que pretenda seguir generando empleo y en nuestro caso abonando a nuestras haciendas para que se pueda pagar nuestra sanidad nuestra educación o nuestras rgi

facilitar su crecimiento tener acceso a financiación adicional para plantearse proyectos de crecimiento y en definitiva dotarse de mayor notoriedad en los mercados es feo hacer eso les parece mal salir al mercado y pedir financiación para un proyecto estratégico y con potencialidad de crecimiento

respecto al tan denostado plan para salir a bolsa poco tenemos que decir salvo que es un plan impulsado y respaldado por el consejo de administración de una empresa privada

deberían de sentarse en aquel consejo o en cualquier otro de cualquier empresa privada de euskadi para ir indicando que es lo que tienen o no tienen que hacer es ese

intervenir en los consejos de administración y en cualquier caso

intrínsecamente perverso estoy seguro de que sin estar en el consejo de administración

a bolsa haya reportado del orden de sesenta a setenta millónes de euros algunos de los cuales por cierto son de los famosos incentivos a directivos y empleados de euskaltel por cierto modelo absolutamente normal en el funcionamiento de los fondos de inversión lo cual no quiere decir que

y que no tiene por qué quebrar la idea de promover empresas erradicadas en el país

creadoras de empleo y abiertas al mundo tanto en su captación de socios como en sus posibilidades expansivas cualquiera puede tener su razonable opinión personal que no debería transponerse a posicionamiento político cuando las cosas se han hecho con la coherencia

competitiva con tamaño relevante y que tenía expectativas de éxito futuro pero al tiempo salir a bolsa era un proceso imprescindible para continuar existiendo en definitiva y de ahí la transacción alcanzada por el grupo socialista que por cierto agradezco el esfuerzo realizado que pretende trasladar la mayoritaria opinión

para crear empleo de calidad invertir o dar cada día mejores servicios siempre en coherencia con el mantenimiento de la vinculación con euskadi y con la sociedad que impulsó su nacimiento y maduración respecto a la concreción de su moción no entendemos de ninguna manera que se haya modificado el rumbo que ha tomado la empresa

se planteó como una inversión pública en un sector en el que no había capacidad

algún momento pudiera ser absorbido y recrecido por el sector privado eso es lo que se ha hecho luego no parece reprochable

independientemente de que en este estado ya se ha valorado no tenemos nada que reprochar lo que se trató de una decisión particular de un consejo que no contraviene ninguna norma y que pretende involucrar a los directivos en el destino de la empresa

simplemente señalarle que la primera no es fundación pública

como fundación no pública participada por el gobierno solo participada

en una especie de castigo infantil de ikastola de envío al rincón el gobierno vasco poco puede hacer con el asunto pues porque aparte de que no lo comparte no tiene capacidad de castigo en ese ámbito vuelvo al principio

tras contextualizar el proceso resulta más comprensivo

el gobierno vasco comenzó en los años noventa del pasado siglo a invertir con dinero público en futuro en telecomunicaciones y como también se avisó desde un principio a medida que se fue concretando un sector privado capaz de absorber lo creado

se lo transfirió como se ha hecho en otras ocasiones con otras tantas empresas y es que nosotros mantenemos una coherencia

y es que además la coherencia acerca a la serenidad

que según gandhi consiste en poner de acuerdo pensamientos palabras y hechos que es

y hoy ahí está ahí lo tenemos un proyecto estratégico internacional sólido y prestigioso y usted se empeña en decir que se han hecho mal las cosas
pues usted sabrá muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

digamos que no tenía por qué no estar de acuerdo con ninguno de esos puntos

que salvo alguna cosilla podríamos estar más o menos de acuerdo

me van a permitir a mí porque nosotros sí apoyamos en su día y autorizamos

la cesión de activos del gobierno vasco a la empresa euskaltel

y quiero recordar qué ocurría en aquel agosto del año dos mil doce porque fue en agosto cuando se reunió la comisión de economía

había una empresa euskaltel con cerca de seiscientos trabajadores

con una multa de doscientos veinte millónes de euros que pendía sobre la empresa por lo tanto la empresa tenía un problemón

el sesenta y ocho por ciento de las acciones de esta empresa que era un problemón y que tenía que deshacerse de gran parte de ese paquete de acciones porque sino consolidaba su balance porque era una filial de la empresa y el balance no estaba para hacer grandes cosas confluían estas cosas y nosotros evidentemente

entre otras cosas porque nos pensábamos que era lo bueno para la empresa era lo bueno para los trabajadores y era lo que había que hacer y evidentemente nosotros estamos de acuerdo en que las empresas ganen dinero mucho que los directivos ganen dinero mucho y que los trabajadores ganen dinero mucho no nos parece mal que la gente gane mucho dinero sobre todo si se lo trabaja y se lo merece

no vamos por ahí pero alguien tendrá que comprender

que digamos con fondos públicos se revaloriza esa empresa claro tres años después son millónarios pues alguien dirá hombre aquí hay algo que falla y a mí me parece muy bien que salga

de muchas maneras y de muchas fórmulas alternativas y que crezca mucho y que se convierta en una superempresa y que en vez de seiscientos que ya no son seiscientos fueran mil doscientos pero aquí hay algo que no cuadra

es decir cuando en este parlamento se plantean las cosas razonablemente los grupos apoyamos razonablemente esas cosas cuando el resultado final te choca y a mí qué quieren que les diga a mí me choca a

prácticamente sean el precio de la transferencia de la red del gobierno vasco

se hizo cuando menos raro y a mí me consta que el gobierno vasco no conocía esos contratos

y desde luego en el parlamento vasco los desconocíamos ahora bien kutxabank socio mayoritario

y eso aquí se ocultó se ocultó aquí en este parlamento y a mí eso me parece mal

euskaltel sea una empresa de éxito y les repito que ojala gane mucho más dinero cree mucho más empleo y la gente viva fantástico de bien

estarán conmigo que cuando este parlamento en el mes de agosto de prisa y corriendo tiene que reunirse para hacer esto

y repito porque yo he estado allí y me pareció bien y lo aprobamos

que el premio de aquellos gestores que para salvar a la empresa hubo que hacer esto sea en fin que me da igual que lo reinviertan en acciones de la propia empresa o sea como usted comprenderá a mí eso me da absolutamente igual

y eso no tiene remedio y por lo tanto a mí que reinviertan en su

dos mil doce pero lo hicimos nosotros

digo todos los vascos somos los que invertimos allí y no me parece que hayamos pillado cacho en los bonos eskerrik asko

bueno señor tellería estaba esperando ansioso su cita celebre del debate de hoy

sobre la coherencia verdad en el punto tres de su enmienda dicen que las empresas

con la construcción de un modelo social más igualitaria y justa en términos sociales y económicos

les pido coherencia que cuando ven que una práctica empresarial viola de forma evidente

se atrevan a criticarlo porque aquí

vamos a ver la secuencia de acontecimientos desde el año dos mil doce incluso un poco antes cuando este parlamento

con agostidad y alevosía la red de fibra acuerda venderla que luego se materializa más tarde acuerdan vender la red de fibra y acuerda vender su participación

es decir todas las vulneraciones de derechos laborales

todas las externalizaciones todo el tensionamiento de la red distribuidores

y ustedes venden la salida a bolsa como la única opción para las empresas y no es la única opción de repente a veces doscientos millónes parece que

si la empresa está muy poco endeudada si puede pedir doscientos millónes usted dice tienen necesidad de capitalización

que las empresas cojan dinero para eso pero no tenía la única opción de la bolsa tenía otras empresas y ahí se ha visto han pedido un crédito de berrehunmillónes y ha dicho kutxabank y el fondo internacional cien para ti y cien para mí para el bolsillo no para invertir en el país

y se reparten doscientos millónes alegremente de los cuales este país no ve nada

primero vende la participación pública y luego dicen que es una empresa cien por ciento privada y que no pueden hacer nada

ya ha dicho claramente que ese ha sido su modelo ahí sí que la agradezco la coherencia y la claridad

en su enmienda inicial cuando decía el parlamento insta al gobierno vasco a continuar impulsando la creación de nuevas empresas

para que una vez sean viables animar a la participación en su adquisición y gestión

cuál es su modelo de lo que debe ser la inversión y la participación pública en las empresas crear empresas apostar arriesgar

perdiendo en algunas empresas dinero público pero en otras en las que sale bien se coge se privatizan y se entrega el beneficio al sector privado

cuál es la política y cuál es la inspiración del gobierno vasco

la salida de euskaltel a bolsa como decía no se puede desligar de todo lo anterior yo he dado aquí una serie de datos que no se han cuestionado no se han desmentido bueno de hecho ni se han aludido

y eso datos significan que ha habido toda una práctica dirigida a esa salida a bolsa que no se puede separar el hecho de salida a bolsa de todo lo que ha venido anteriormente

y eso es una actitud que realmente creo que merece el rechazo de esta cámara si queremos ser coherentes coherentes incluso con lo que ustedes en su propia enmienda defienden que las empresas tienen que promover también un modelo social más igualitario y justo y cuando aquí se ha vulnerado de forma flagrante y evidente esos principios que ustedes dicen defender

no está tan mal era necesario no tenemos nada que decir porque es una empresa privada

sobre la salud de la empresa euskaltel efectivamente pero vuelvo a repetir

es el mismo debate que tenemos sobre kutxabank que los gestores de kutxabank han comprado caja sur se han metido en un marrón que ni ellos mismos saben del cual salir que no es que sean muy buenos y por eso kutxabank esté tan bien

es que hay una sociedad que las percibe como diferentes y por eso está dispuesta a participar y a tener una relación con esas empresas que no se tiene con cualquier otra empresa

y si vamos por el camino de que esas empresas pierdan ese plus ese plus de diferenciación de arraigo de hacer las cosas de otra manera de generar un valor añadido para el país

es cuando la gente va a perder la confianza y cuando esa posición de mercado que no se han ganada gracias a la gestión de genios empresariales sino a esas características esa

son este tipo de actitudes este tipo de prácticas temerarias este tipo de prácticas empresariales agresivas las que pone en peligro a empresas con arraigo en este país y no defender que cumplan una función y una responsabilidad social

sí gracias presidenta bien pues después de este debate

como partido comprometido con el país y su progreso económico que los socialistas apostamos por crear e impulsar empresas que sepan crecer y desarrollarse por sí mismas

y los socialistas apostamos igualmente porque la dinamización y modernización de nuestra economía que se derive de este impulso y respaldo a la actividad empresarial redunde en beneficio de un mayor bienestar y mayores niveles de igualdad en la sociedad vasca

y esto exige una implicación seria de los poderes públicos para que los avances económicos y el aumento del empleo del bienestar y de los derechos sociales vayan de la mano

a que lo económico y lo social mantengan ese desequilibrio creciente que se observa en estos últimos tiempos y esto vale también para euskaltel como empresa que ha gozado desde su mismo origen con un apoyo especial del sector público es lógico por tanto que los poderes representativos de este país tengan algo que decir sobre la responsabilidad futura

sobre todo cuando su dirección adopta decisiones muy cuestionables que por su magnitud no pueden explicarse a una sociedad que está sufriendo y padeciendo los efectos de la crisis

es también necesario para corregir tendencias que hieren cada vez más la sensibilidad

mal el control democrático tiene que penetrar también en las empresas por muy privadas que estas sean cuando se haya creado fundamentalmente con patrimonio público

que la marcha empresarial de euskaltel esté bajo la lupa de la opinión pública bajo la lupa de la ciudadanía y bajo la lupa de las instituciones de euskadi y de hecho

ha producido efectos positivos en la medida en que ha hecho posible

de sus bonus en acciones de la propia empresa hay algo que tenemos muy claro y es que la ausencia de controles y de regulaciones políticas también en el ámbito de las empresas no resuelven problemas

y crea además situaciones de injusticia difícilmente tolerables

con la enmienda que los socialistas hemos presentado es devolverle a la sociedad vasca una cierta confianza en el sector empresarial al exigir que las prácticas empresariales

pero deben también ser consecuentes con la construcción de un modelo de sociedad más igualitaria y más justa como decía antes en términos económicos y en términos sociales

el compromiso en este caso que euskaltel y sus equipos directivos tienen con esta sociedad por el apoyo que se les concedió con este patrimonio público en su origen

y por exigir que en sus decisiones estratégicas mantenga su vinculación con euskadi y un compromiso con la sociedad que se traduzca como decía también en creación de empleo y en una apuesta por la innovación que se establezca un clima unas condiciones laborales en la organización de calidad porque disponen de medios económicos para ellos no hay excusa por eso entendemos los socialistas que esperamos que la enmienda que hemos logrado transar sirva de ejemplo en la medida en que así llegue al modelo empresarial vasco

no vuelvan a ocurrir en sectores estratégicos y en sectores emergentes porque de ello depende el crecimiento de la economía vasca y sí miramos hacía otro lado

esas decisiones que se adoptaron en aquel mes de junio al inicio de las intervenciones no podemos olvidarnos que el crecimiento económico

el hecho de externalizar determinados servicios no supone que se descapitalicen empresas serán maneras diferentes de verlo pero es así

la confianza que se perdió y que situaciones como estas no vuelvan a darse

en el modelo empresarial vasco sean de verdad principios y valores que se lleven adelante y no como ha ocurrido recientemente muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

mahaiburu andrea legebiltzarkideok arratsalde on berriro yo no estaba expectante señor casanova sobre lo que iba a decir

usted había presentado la moción y el otro día la interpelación sí estaba esperanzado

le convenciera y cambiara su posición pero he visto que no que no ha sido posible y se ve que mi capacidad de seducción ha bajado enteros en la bolsa de valores pero bueno que le vamos a hacer lo he intentado

por un lado sigue insistiendo qué modelo fundacional se ha quebrado

existía un modelo un modelo de empresa que sí es cierto el problema no es un problema es la realidad de la diversidad que hay aquí es que tenemos modelos diferentes yo he contado el mío y el nuestro

en impulsar empresas desde el carácter público cuando no hay un sector privado capaz de abordarlo y en un momento determinado traspasarlo a un justiprecio

podemos discutir lo que usted quiera si recupera o no recupera la intencionalidad es esa

su modelo es la funcionalización de todos los elementos de la sociedad sabe quien tenía el modelo público de telefonía

que además de tenerlo público aprovechaba me imagino para escuchar todas las conversaciones que teníamos

porque claro que el modelo es diferente y nos encontraremos ahí pero yo creo que es más transparente y más lógico explicar a la ciudadanía su modelo el mío que le explico y no hacerlo por la pasiva como usted lo hace

algo que pueda parecer un modelo explíquenlo díganos claramente que quieren una euskaltel pública

y una sí sí todo público todo con funcionarios y

no criticando cada vez que nosotros hacemos algo sino creando ustedes creen

esa es la cuestión porque en el fondo y por esa visión de su modelo más que molestarles los bonus de los directivos que les molestan y me parece lógico

porque se pierde el control de lo público más todavía y vuelvo a decir empezó como pública y terminó como privada

no había otra posibilidad por cierto hasta la venta última del dos mil doce digamos la gente que podía pertenecer al entramado actual de eh bildu jamás participó en aquel debate jamás

porque tampoco lo público es garantía de nada mire le sonará

y un fraude multimillónario que puede tener otras implicaciones de otro tipo de lucha por mercado el estado de baja sajonia sabe cuánto tiene

y eso no garantiza que hagan bien las cosas y tampoco ese empeño en que el empleo es de mala calidad el que se ha creado

solo sé que hoy había una asamblea de trabajadores para el convenio colectivo

como hayan aprobado eso alguien se va a comer las patatas de la calidad del empleo es decir en definitiva la presencia pública en las empresas estratégicas o no y que nosotros no repudiamos para nada no es garantía tampoco de nada no es garantía

su modelo de empresa su modelo se sociedad su modelo público de cosas
les espero y debatiremos muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

sí muy brevemente señoría efectivamente

y terminó como privada y en el ínterin pues algunos se hicieron millónarios y eso es lo que a nosotros no nos cuadra con todo el esquema del planteamiento que nos acaban de defender hoy porque evidentemente nosotros sí estamos de acuerdo con ese modelo de que tiene que ser empresas privadas y de que tienen que salir a bolsa si les interesa porque así acceden a más recursos pero lo que

es que en el trasvase de pública a privada esos que lo público les había puesto se hagan millónarios con las aportaciones de lo público que es lo que revaloriza a la empresa y por eso nosotros tenemos la discrepancia

en esta cámara de recortes de los derechos de los trabajadores en una reforma que afecta a las mutuas y lo que es también muy preocupante además abre una brecha para favorecer la privatización del sistema público de salud nos oponemos a que las mutuas entren en el ámbito de la sanidad pública ya que esto puede suponer que se vulneren los derechos de los trabajadores

que se deslegitime al médico de cabecera y a la inspección médica del sistema público de salud que se genere una gran burocracia para justificar recortes de derechos y que se permita que sea el propio empresario el que determine cuándo y cómo da el alta y baja

los socialistas vascos no podemos estar de acuerdo tampoco con que las mutuas entren a controlar los partes de alta y baja de los trabajadores es decir la asistencia sanitaria derivada de la enfermedad común para nuestro grupo parlamentario eso es

y todo ello es lo que permite la reforma que se aprobó en diciembre por el gobierno de rajoy con el acompañamiento del partido nacionalista

esta reforma que entró en vigor el uno de enero del dos mil quince favorece la privatización del sistema público de salud y supone una discriminación de facto en el trato que se dará desde la sanidad a todos los ciudadanos

y quienes no y el partido que gobierna en euskadi vista su enmienda no se propone enmendar esta lesión de derechos

es a gestionar el recorte el pnv nos propone asumir la competencia de este nuevo atentado contra los derechos de los trabajadores

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y que tras la reforma pasan a denominarse mutuas colaboradoras con la seguridad social

asociaciones sin ánimo de lucro integradas por empresarios sin perjuicio de que su control y tutela lo tenga que realizar la propia administración sin embargo las funciones que realiza son de naturaleza pública gestionan recursos públicos

como asociaciones de empresarios que son sin embargo este cambio pretende ocultar la privatización del ámbito de la gestión de la seguridad social y la asistencia sanitaria así como facilitar la expansión a otros ámbitos de la acción protectora de las mutuas que hasta ahora no cubrían como las contingencias comunes de paso

el gobierno de españa se ha comido más del cuarenta y cinco por ciento de la hucha de las pensiones en esta legislatura una hucha que solo se va a mantener

son empleados pero empleados con capacidad de cotizar no esas cifras que sirven para maquillar los datos del desempleo pero que cobran salarios tan ínfimos

una hucha que se podrá mantener si el conjunto de trabajadores mantienen salarios dignos no si se empobrecen como permite la reforma laboral de rajoy y por qué digo esto pues bien la reforma que afecta a las mutuas por si fuera poco más dinero del fondo de pensiones porque incrementa el número de reservas de las mutuas y sus márgenes de acumulación en detrimento del fondo de reservas de la seguridad social sumo y sigo aprueba también nuevas retribuciones para los responsables de las mutuas

y por añadidura en caso de quiebra permite que el gobierno acuda al rescate de determinadas mutuas utilizando para ello dinero proveniente de la seguridad social esto es

que tienen en sus manos la garantía de derechos de salud de los ciudadanos

se van a pagar con el dinero de todos los ciudadanos porque proviene de las cotizaciones de la seguridad social esta reforma de gran calado también afecta al funcionamiento de las mutuas como servicio de prevención

con repercusiones en el sistema vigente de prevención de riesgos laborales

en las sociedades mercantiles de prevención a partir de ahora de obligarlas a externalizar el servicio se les impone el plazo perentorio de un año para separar el patrimonio vinculado el servicio de prevención de la mutua con el despropósito que esto supone en una época de crisis

llevar a malvender dicho patrimonio comprometiendo el patrimonio de la mutua a través de decisiones precipitadas

lo cual repercutiría negativamente en el patrimonio de la seguridad social donde se integra el patrimonio de las mutuas una decisión de este calado debería de haber sido precedida por un diálogo social y este no ha existido es decir lejos de mejorar la gestión y la transparencia vamos en sentido contrario permitiendo

algo a lo que nos tiene muy acostumbrados el partido popular

en lo que los ciudadanos nos demandan todo lo contrario nos demandan una mayor transparencia y un mayor rigor en la gestión de los servicios públicos es un resumen de la suma de despropósitos y recortes de derechos

y expresamente apoyados por el partido nacionalista vasco sabemos y es fácil de entender aunque no de compartir el argumento del gobierno de españa de que lo que pretenden con esto es conseguir que en el control de las altas y las bajas por enfermedad común suponga reducir un absentismo los socialistas sabemos que esto es una auténtica falacia pues lo que realmente pretenden es fortalecer el papel de las mutuas los socialistas en madrid y en vitoria seguimos pensando que las mutuas deben centrarse

la atención de riesgos profesionales el pnv sin embargo en madrid y en vitoria muestran su intención confirman el fondo y reclaman la gestión de estos despropósitos distritos como si por llevar label vasco

en euskera o en castellano esto es un atentado contra

lo que hacen es ampliar la gestión a las contingencias comunes

las bajas médicas con la única finalidad de conseguir una reducción del gasto

decide con esta reforma huir del consenso político y social

que pueda garantizar que reformas de esta gran trascendencia sean de futuro y por tanto tengan un carácter de permanencia no ha sido así

no han buscado ese consenso y amparándose en su mayoría absoluta en españa hacen una reforma

y a la salud de los trabajadores de este país por eso por todos estos despropósitos es una ley que ha nacido con fecha de caducidad el partido socialista manifestó ya en diciembre en el congreso de los diputados nuestro compromiso de cambiarla y ahora lo reiteramos los socialistas vascos hoy en este parlamento porque en la próxima legislatura que se inicia a partir de finales los socialistas lo vamos a cambiar por el contrario los socialistas vascos defendemos una sanidad pública vasca para todos los ciudadanos con independencia de que sean trabajadores o no y gestionadas por una entidad pública

porque lo que debe cuidar lo público es la salud del trabajador no los intereses de los empresarios esto es lo que nos diferencia

y espero que de aquí salga un acuerdo defendiendo la iniciativa socialista para nosotros lo más importante es expresar el rechazo

de salud así como a la discriminación de ciudadanos según si tienes la condición de trabajador o trabajadora o no eso

lo que le compete no lo que hace su partido en madrid y lo que le compete es defender los intereses y derechos de los vascos de todos los vascos

y los servicios públicos de salud que permitiría la realización

médicos que lógicamente va a suponer un gasto adicional para la sanidad vasca se puede conseguir reducir las listas de espera pero tendrán prioridad por tanto y más posibilidades los que tienen la condición de trabajadores o trabajadoras

que no tienen la suerte hoy en día de tener esa condición no supone esto de nuevo una discriminación en el trato según si el ciudadano tiene la condición de trabajador o no a la hora de ser atendido pues nosotros creemos que sí lo supone no existe la obligación de suscribir dichos convenios

voluntaria de las mutuas así lo establece la norma

no debe suscribir voluntariamente dichos convenios y así se impedirá una privatización encubierta de la sanidad pública utilizada por las mutuas en su propio beneficio que además puede repercutir en el perjuicio a los servicios a los que estos centros deben estar destinados

que saliera adelante el compromiso de que este gobierno

para no firmar los convenios con las mutuas en los términos contemplados por la reforma legal que rechazamos o lo que es lo mismo que el gobierno vasco no contribuya al recorte de derechos a la salud de los trabajadores de euskadi

nuestro grupo asume la totalidad del estatuto también el artículo que permite la gestión económica de la seguridad social pero nos negamos rotundamente a que las competencias

no queremos asumir una sola competencia que suponga recortar derechos sociales defendemos asumir competencias para reforzar los derechos

por eso defendemos nuestra iniciativa y pedimos para ello el apoyo de los diferentes grupos nos parece la más coherente completa y sensata y que coincide en su totalidad con

la enmienda planteada por el grupo upyd y que coincide también en gran parte con la propuesta del grupo eh bildu en el que

pedían la no suscripción de convenios y conciertos con las mutuas para la utilización de recursos de

también en su punto tercero la enmienda del partido

y parte de la de bildu piden también la transferencia del régimen económico de la seguridad social y la competencia de las mutuas que tengan su domicilio

autónoma vasca no dándose cuenta que eso

es muy complicado porque todas las mutuas tienen por norma en el artículo cincuenta y ocho punto uno de la ley general de la seguridad social

nacional por tanto no podemos estar de acuerdo con la enmienda presentada por su grupo en este sentido y por eso les pedimos el voto a favor de nuestra enmienda que evitaría esa

de la seguridad social y la suscripción de futuros convenios entre las mutuas y el sistema público de salud al partido nacionalista vasco

todavía están a tiempo y al partido popular obviamente no le pido que se sume a la propuesta porque probablemente saldrán ustedes seguramente a defender que esta reforma es muy buena para los trabajadores y desde luego está muy claro que no lo es nada más y muchas gracias

una reforma de la ley de seguridad social que afecta a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales denominadas

mutuas colaboradoras con la seguridad social y se aprobó con los votos del partido popular del partido nacionalista vasco

nosotros presentamos una enmienda de totalidad y votamos en contra de aquella ley

sus razones para oponerse a esta reforma y nosotros en general compartimos sus preocupaciones y temores expuestos en su justificación

va a gobernar españa y por lo tanto no debería preocuparse tanto van ustedes a arreglarlo todo y además en poco tiempo con lo cual

aunque esta iniciativa no salga adelante no se preocupen ustedes que en cuanto lleguen al gobierno van a reformar el país y van a hacer además todo lo que no hicieron antes

mutuas de accidente de trabajo y enfermedad profesional tienen su origen legal en el texto articulado de la ley de bases de la seguridad social aprobado por decreto

el cual las definía como entidades privadas colaboradoras en la gestión de la seguridad social

de naturaleza profesional desde su origen hasta la actualidad la regulación de las mutuas ha sufrido una serie de reformas de bastante calado como son la consideración de las primas como cuotas de seguridad social a todos los efectos

y la ampliación de competencias a otras prestaciones de seguridad social

en la reforma de dos mil catorce se daba una especial importancia a la regulación de los siguientes aspectos el régimen económico financiero y la constitución de reservas algunos aspectos referidos a los órganos de gestión la regulación de la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal derivada

comunes cambios en la prestación de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia y también algunos cambios en materia de prevención de riesgos laborales no quisiera convertir esta

en una cámara de segunda lectura de lo que hace el congreso de los diputados pero en todo caso me voy a referir a qué es lo que decíamos nosotros

esta ley quisimos explicar cuáles eran lo que nosotros consideramos digamos los cinco aspectos negativos

en este cambio legal las cinco preocupaciones las cinco objeciones

votar en contra de esa ley para presentar la enmienda de totalidad y después para votar en contra de la ley el primero decíamos tiene que ver con el cambio de denominación de estas instituciones

de forma genérica mutuas colaboradoras de la seguridad social estas mutuas decíamos nacieron en un ámbito muy específico el ámbito profesional y han ido adquiriendo más y más competencias de la seguridad social esta nueva denominación daría la sensación de que en el futuro se quiere seguir por esa vía de que

de la seguridad social y decíamos que efectivamente nos parece un error y por tanto creemos que en la denominación de estas instituciones debería quedar más limitado cual es su ámbito de competencia

la segunda cuestión tiene que ver con el régimen económico financiero es decir con los gastos de administración estos gastos de administración han sido tradicionalmente más altos en las mutuas que en las entidades gestoras de la seguridad social y estos mayores gastos han dado lugar a casos de mala gestión e incluso

que han saltado a los medios de comunicación por cierto esto

las mutuas son más eficientes que las entidades gestoras de la seguridad social

y limitarse más porque hay una referencia clara que son las entidades gestoras de la seguridad social que se caracterizan por su eficiencia tercera cuestión en el proyecto de ley se regulan los órganos de gobierno de las mutuas creemos decíamos en primer lugar

es demasiado laxo para las personas que participan en los órganos de gobierno de esas entidades nos sorprende que no se prevea la participación de los trabajadores

dado que en último término son los trabajadores los que reciben los servicios de las mutuas habría que regular mejor esas comisiones de control si queremos que desempeñen

la cuarta cuestión tiene que ver con la gestión de la prestaciónde la incapacidad temporal por contingencias comunes y decíamos hay una cierta presunción de culpabilidad

que se piensa que puede estar no yendo a trabajar sin estar enfermo de verdad y hay una cierta presunción de complicidad del médico del sistema público de salud que parece que si no da el alta no es porque siga enfermo el trabajador sino porque no tiene prisa porque

y para evitar esos supuestos problemas se les dan a las mutuas unas competencias excesivas de forma que puedan controlar las bajas desde el primer día al siguiente de la emisión o puedan emitir propuestas nos preocupa decíamos un tema que se ignora que es una realidad social hoy en españa hay esa obsesión por el trabajador que está bien y simula una enfermedad

pero en nuestra realidad social se está dando el caso contrario es decir trabajadores con empleos muy precarios con miedo a perder su puesto de trabajo y que van enfermos a trabajar como consecuencia de ese miedo esto ocurre más que lo otro personas que efectivamente están enfermas pero sin embargo no van a trabajar por miedo a

empleo finalmente la última preocupación tiene que ver con los convenios que van a poder realizar las mutuas con el servicio público de salud para hacer pruebas o tratamientos a los trabajadores que están en incapacidad temporal si seguimos por esta vía

en dos subsectores un sistema de salud destinado a los trabajadores que se traten en los hospitales de las mutuas y el resto de ciudadanos en el sistema público de salud que el derecho a la salud es un derecho universal y que nuestro sistema de salud debe mantener su homogeneidad en fin estos son los argumentos que planteamos en aquel debate

de la ley el problema de las mutuas su existencia y participación como agente en las prestaciones de la seguridad social no es nuevo y precisamente el partido socialista en los años que estuvo gobernando nunca dio pasos para limitarlo ni eliminarlo quizás lo hagan ahora en cuanto lleguen al gobierno

supongo el asunto en todo caso de mutuas tiene mucho fleco y discusión y profundizando lo cierto es que hay muchos matices que hacer

y cuatro la propuesta recogida en el punto tres insta a que no se hagan conciertos con las mutuas y ello para fortalecer el sistema público de salud el asunto es que mientras las mutuas existan a pesar de tener con ellas una posición crítica reformadora y reformista hay que reconocer que tienen recursos muchos de ellos especializados y que prescindir de ellos no parece que tenga demasiado sentido y en relación al punto cuatro en fin lógicamente nadie puede estar en contra de lo que se propone invertir evidentemente está bien ahora bien lo que sigue en la propuesta es un poco incorrecto

económicas por bajas en contingencias comunes y la gestión completa de las contingencias profesionales pagándose por ello las cuotas correspondientes

espinoso por lo que cualquier cambio exige creo debate acuerdo y cambios donde corresponde es decir en el congreso de los diputados me parece que un tema como el que se plantea

plantearlo a través de una proposición no de ley me parece excesivo por eso nosotros estaríamos dispuestos en concreto yo a votar a favor de los primeros dos puntos y me abstendría en lo que se refiere

tres y cuatro por ello votaría a favor de los puntos uno y dos pediría la votación por puntos nosotros en nuestra enmienda hemos

eso que este parlamento manifieste su rechazo a la reforma y que pida su derogación entrar en otros asuntos espinosos y hacerlo
a través de una pnl me parece isiltasuna mesedez me parece ciertamente excesivo más allá de que

los pueda compartir eskerrik asko maneiro jauna

sailburuak arratsalde on denoi en este debate desde nuestro grupo parlamentario nos gustaría antes de defender nuestra enmienda puntualizar tres cuestiones y para ello vamos a seguir el esquema planteado en origen porque yo lo considero así en origen

osoko zuzenketa aurkeztu zuen lege proiektu hori gobernuari itzultzeko presentamos esa enmienda al ser ignoradas las competencias autonómicas previstas en nuestro estatuto en materia de prevención de riesgos laborales así como las competencias en materia de sanidad y específicamente en la gestión de determinadas contingencias como la incapacidad temporal de entrada esto ya impedía taxativamente que nuestro grupo pudiese respaldar su contenido

con el mandato para la reforma del marco normativo de las mutuas previsto en la ley veintisiete barra dos mil once pretendiéndose dar en el proyecto de ley una orientación al modelo de mutuas absolutamente contrario a lo normado y que fue ampliamente consensuado

instando a una revisión integral del proyecto después de no ser aceptadas nuestras enmiendas en el congreso las dificultades aparentemente insuperables fueron objeto de remoción en el senado curiosa práctica esta del partido popular

el adecuado funcionamiento de las mutuas y la gestión eficaz que han demostrado tradicionalmente en relación con las contingencias que protegen sería injusto olvidar su preexistencia a la seguridad social desde el año mil novecientos su funcionamiento en colaboración con el régimen público y la creación de un fondo

al propio fondo de reserva de la seguridad social como podemos observar nuestro planteamiento en cortes generales es algo muy diferente a la imagen que ustedes dos han querido trasladar hoy aquí y a la que se la trasladaba en sus

sin embargo gracias a nuestro grupo parlamentario en madrid la contradicción inicial del gobierno del estado se subsanó

a esto le llamamos dar batalla parlamentaria en madrid la segunda de las cuestiones la garantía de los derechos sanitarios

universalidad solidaridad equidad paridad participación ciudadana y sostenibilidad

al punto segundo de sus textos no sé qué parte del principio de universalidad no entienden realmente atendiendo a la defensa de estos principios el pasado veintinueve de mayo

sobre esta cuestión en primer lugar determinó las cuatro áreas de impacto negativo de esta reforma en el sistema de salud tiempos medios electrónicos pruebas diagnósticas y tratamiento y convenios y acuerdos y en segundo lugar planteó actuaciones concretas para hacerles frente en el caso de que se produzcan

porque como dice la señora sanchez en la justificación de su iniciativa ya que esta reforma pueda implicar

no quiere decir que necesariamente implique el consejero nos demostró nos demostró previsión el gobierno vasco tiene previstas estas posibilidades estas implicaciones nos demostró voluntad de seguir manteniendo la gestión de la incapacidad temporal por contingencia común

y nos dio nos lanzó una imagen de reivindicación de la necesidad de abordar el traspaso del régimen de la seguridad social a euskadi incluyendo las mutuas en su supervisión y control tercera cuestión las acciones de defensa del sistema y en esta tercera cuestión la consideramos fundamental por su importancia

puntos de la iniciativa a la señora zulaika a los que hoy también ha hecho

de naturaleza extra estatutaria de establecer de manera unilateral y dice exigencia de desarrollo de un ámbito de protección social que garantice la competencia total plena de la seguridad social una

para evitar ingerencias del estado ello lo debería usted saber bien es imposible pero no lo es la reivindicación de un traspaso del régimen económico de la seguridad social

la autorización y control de las mutuas llamémosle vascas

nada nace de cero en esta materia ni hay papel en blanco ni hay capacidad financiera de nacer de cero en esta materia parece que para ustedes no existe nada en este concreto asunto hasta que a ustedes

la brillante idea de escribir esta proposición no de ley pues está muy equivocada señora zulaika si existe existe un artículo dieciocho punto dos y una disposición transitoria quinta

referencia a esto es mucho es poco para nosotros es mucho y lo que sí sabemos es que sin la gestión mediante un traspaso digno y coherente del régimen económico de la seguridad social

no es posible construir un marco vasco de protección social ni un modelo vasco que establezca con claridad el quehacer de las mutuas que se habla en la proposición no de ley en fin

dónde está su modelo alternativo lo que decía el señor tellería hace un rato dónde está ese modelo creíble real eficaz

un transito hacía mayores cotas de autogobierno nuestro grupo cree

presentamos en su día y defendemos hoy nuestra enmienda una enmienda que sigue un esquema un camino muy diferente al suyo con carácter principal requerimos al gobierno del estado a cumplir la ley

esta transferencia deberá incluir las funciones de tutela autorización supervisión y control incluido su régimen financiero un camino muy diferente justo el inverso ustedes empiezan por el tejado nosotros cimentamos y luego vamos hacía arriba como siempre se ha construido en este país por cierto

con la contra argumentación de siempre del partido popular basado en dos pilares el concepto de caja única y la balanza financiera de la seguridad social en euskadi señora llanos la caja única no existe

es un artificio jurídico es una construcción extraconstitucional creado por ustedes en una ley ordinaria recentralizadora han ido creando este artificio esta cortina de humo

el posterior seudoprincipio de la unidad de caja hasta sacarse de la chistera el concepto de caja única no existe la caja única y hoy tiene en este debate otra prueba la mera existencia de las mutuas es una clara evidencia de la inexistencia de caja única

social en euskadi ya se ha desarrollado estos días incluso en el pleno de política general del pasado día veinticuatro solo decir que el mero hecho de que la mencionen quita razón a la anterior argumentación porque si ya hay consolidada esa caja para qué siguen argumentando en relación a la balanza toda esta

un objetivo con dos partes por un lado disimular maquillar justificar el incumplimiento de una ley orgánica durante treinta y seis años nuestro estatuto

en su relación con la ciudadanía vasca a los órganos gestores de la seguridad social estatales algo consustancial al ejercicio de nuestras competencias según nuestro estatuto incumplimiento de ley de lo que nunca quieren hablar esta es una cuestión de las que no les gusta hablar no nos hagan el favor de protegernos

preocúpense por cumplir la ley y déjennos utilizar los instrumentos que nos corresponden por historia y por ley para terminar señora zulaika y recordando otro debate con la señora arrondo hoy aquí presente si bien referido a otra materia

diferente materia pero debate referido a los mismos conceptos

del debate una pregunta qué salidas qué soluciones se podrían plantear para superar aquella situación ese día le dimos la solución a la señora arrondo hoy le damos la misma solución a usted la solución

de nuestro estatuto por este camino daríamos solución a lo relacionado con las mutuas con la jubilación de las trabajadoras a tiempo parcial y a muchas muchas

gracias señora presidenta buenas tardes a todos bien estamos aquí ante

porque esta iniciativa originalmente se presentó por eh bildu en esta cámara no se pudo defender porque fueron expulsados los representantes de eh bildu

y como dice el señor maneiro pues estamos aquí ante una iniciativa de segunda lectura

de utilizar el parlamento vasco como esa segunda instancia del congreso de los diputados lo que no se consigue allí porque no se tienen los votos suficientes

a ver si se obtiene una victoria aunque sea meramente simbólica

porque es una competencia del congreso de los diputados pero bueno que algunos con esas victorias

se hace también referencia a que se utilizó allí los votos el rodillo o la mayoría absoluta para luego acto seguido decir que se había aprobado con los votos del partido nacionalista vasco

y la verdad es que este tema se ha debatido profusamente se ha debatido en el congreso de los diputados en pleno en ponencia en la comisión de empleo en el congreso en la comisión de empleo en el senado en el pleno del senado y termina su andadura efectivamente el diecinueve de diciembre pasado con su aprobación definitiva en el congreso

en el senado se aprueba esta ley que lo que está relacionada es con el régimen jurídico de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales

lo que introduce es una regulación para modernizar el funcionamiento de las mutuas y precisamente para aumentar la gestión y reforzar la transparencia

de las distintas prestaciones en beneficio de los trabajadores protegidos se persigue una mejor atención que permita reducir el absentismo laboral injustificado

injustificado el absentismo laboral injustificado se tendrá que reducir porque de esta manera se puede mejorar la competitividad de las empresas y consecuentemente de la economía en su conjunto

con la seguridad social término que parece que también pues causa polémica

en la gestión de la seguridad social y cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional

así como el contenido y forma de ejercicio de las funciones públicas delegadas

esta ley pretende dar coherencia como digo a la naturaleza jurídica de las mutuas a esa dualidad permitiendo que el sector privado participe en la gestión de la cosa pública pero

la titularidad de las prestaciones y la titularidad de los recursos es una reforma pensada para los potenciales trabajadores que puedan verse afectados por incapacidad temporal
y que van a verse beneficiados de una mejor atención mesedez isiltasuna hitz egitera kanpora mesedez y una simplificación de los procesos

consideración una cuestión que se ha pretendido resolver con esta ley es el problema que existía en la demora en la contestación de las propuestas de altas de las mutuas por parte de los servicios públicos de salud pero una cosa

la concesión de la prestación y el reconocimiento del alta o de la baja es una responsabilidad pública una responsabilidad pública

siempre siempre un médico del sistema público de salud

que cuando la mutua considere que el trabajador esté en condiciones de ser dado de alta puede hacer una propuesta de alta a la inspección médica de los servicios públicos de salud y al trabajador dicha propuesta debe de ser motivada y justificada

se ha querido traslucir y se trata de eliminar pero la última palabra como digo la última palabra la van a tener siempre los médicos del sistema público de salud en la exposición de esta propuesta se señalaba

vulnerar los derechos de los trabajadores privatización de la sanidad pública más burocracia deslegitimación del médico de cabecera que sea el propio empresario el que determina cuándo y cómo se le da el alta y la baja por enfermedad común a los trabajadores vamos una visión apocalíptica

que nada tiene que ver con la realidad porque nada de eso es así es verdad

que las mutuas pueden actuar desde el primer día pero eso no significa que van a hacer propuestas de alta desde el primer día no harán las propuestas de alta cuando lo consideren y en cualquier caso como le digo será el médico no sé si es que el médico de salud pública a ustedes no les merece confianza pero será el médico del servicio público el que

por lo tanto no hay ni privatización de la sanidad ni se está recortando derechos de los trabajadores

además de falso es hacer demagogia en el congreso de los diputados hablaban los socialistas de desconfianza que teníamos desconfianza con los médicos de la sanidad pública no no oiga ustedes son los que parece que tienen desconfianza

radicalmente falso que sean otros salvo ellos los que van a dar el alta en este caso han llegado a decir

será si el médico considera que ya no está enfermo porque repito es el médico el que decide el grupo socialista hoy ha vuelto a hablar aquí de privatización de la seguridad social y acusa injustamente al gobierno del partido popular

socialista el que con la ley treinta y cinco barra dos mil diez introducía cambios para evitar la prolongación innecesaria de los procesos de baja laboral por contingencias comunes del sistema de seguridad social hablan de privatización de la sanidad cuando esta ley no atribuye ni una competencia más

en numerosas leyes impulsadas y aprobadas por el gobierno socialista es por las que se concede a las mutuas más competencia en el año noventa y tres la incapacidad laboral por contingencias

en el año dos mil diez el cese de actividad de los autónomos en el año dos mil once la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer este proyecto

gestoras de la seguridad social sino que lo que hace es incorporar y ordenar sistemáticamente las atribuciones que ya tenían las mutuas y que habían sido concedidas fundamentalmente por leyes socialistas no da ni una competencia nueva eso sí aumenta los controles y qué dijo aquí el grupo socialista cuando año tras año el gobierno socialista iba dando nuevas competencias si no extremaba los controles

ustedes todos se oponían decían que era una privatización de la seguridad social cuando se le iban dando distintas competencias a las mutuas y mire si hoy

el descontrol que tenían en la época socialista y lo que pasa es que qué sucede ahora con esta ley sucede lo que sucede con muchas donde dije digo digo diego ahora

cuando lleguen que no va a ser en diciembre por mucho que quieran pero cuando lleguen seguro que entonces les parece fenomenal

darle más yo no sé si es que ustedes hacen actos de contrición lamentándose de lo que han hecho anteriormente

porque todas las cuestiones que salen en todas dicen que lo cambiarían y resulta que lo que van a cambiar es lo que hicieron ustedes mismos pues ya les digo

continua y ustedes hablan de privatizar y si uno lee los debates que hubo en el congreso de los diputados precisamente una de las cosas de las que acusaba el grupo nacionalista es que se habían publicitado excesivamente las mutuas que se le estaba dando un excesivo carácter público y que estábamos interfiriendo desde lo público en el ámbito de lo privado entonces una cosa o la otra una cosa y la contraria

en la justificación de la iniciativa original y con relación al partido nacionalista vasco hombre vamos me ha contestado antes de que yo hable porque no le iba a decir absolutamente nada ni de la caja única ni de

una cosa que ya tenía preparada y otra que se lo digo después de su intervención la verdad es que da gusto hay que ver lo que ha mejorado esa ley con la intervención del partido nacionalista vasco si no hubieran ustedes

ahí donde un nacionalista interviene vamos o sea mejora todo de forma

indiscutible pero sí le diré que su enmienda aprovechando que el pisuerga pasa por valladolid pues yo pido más competencias

pero yo lo que le digo es que si esto era tan vital en el congreso de los diputados no hablaron de reclamar las competencias

hicieron una defensa de algunas de las cuestiones que hoy usted ha expuesto aquí

lo publicita más decía que sentía que las competencias del gobierno catalán estaban perfectamente respetadas

yo comprendo que nunca es tarde y cualquier momento es bueno para reclamar más competencias pero yo desde ahora le digo que no vamos
a votar a favor de su enmienda nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

bueno voy a empezar a centrar el tema voy a referirme en primer lugar a los planteamientos realizados

yo reconozco que la iniciativa la presentaron ustedes evidentemente que no decayó

en el pleno del veintiséis de marzo porque ustedes que no es que fuera rechazada

exactamente porque ustedes abandonaron ese pleno pero esta iniciativa tenía una gran importancia para el grupo socialista y por tanto

la iniciativa porque esta reforma como he indicado anteriormente es una reforma de gran calado no obstante hicimos una labor en aquel momento llegamos a una enmienda transaccional que al final no se pudo votar y es la que yo recogí lógicamente en la presentación de nuestra iniciativa en julio con respecto al planteamiento de upyd señor maneiro yo le tengo

que me tiene usted un poco descolocada porque me ha tenido usted que sí que no

pero bueno me parece muy incongruente que me diga ahora que no le parece bien el punto tercero que se refiere al rechazo

cuando usted en su enmienda a la totalidad señalaba concretamente

de dicha reforma por considerar que su aplicación podría derivar consecuencias negativas para la gestión del servicio de salud

líneas sanitarias para los trabajadores por un lado y para los que no tienen la condición por otro pues

solamente se evita si se pide aquí el rechazo a que se firmen precisamente esos convenios porque a través de esos convenios es por donde se abre la puerta a que se pueda realizar

del sistema de salud y a esa diferenciación entre el trato que pueden recibir

o no tengan esa condición que es lo que he explicado yo en mi primera intervención con lo cual es un poco incongruente porque una cosa va

voy a votar o me voy a abstener en el punto tercero que es precisamente el que recoge ese rechazo a la firma de los convenios para evitar precisamente que esa reforma aquí

en esta comunidad autónoma pero bueno yo espero que se lo piense todavía antes de que llegue la votación del punto tercero no me importa

perfectamente por puntos porque por lo menos saldrá el rechazo a esta reforma y el rechazo a esta discriminación que precisamente conlleva de trato respecto del poder favorecer a los que tengan la condición de trabajadores o trabajadoras respecto de los que no tengan esa

y respecto al planteamiento del partido nacionalista vasco pues ya

por lo cual la división iría tendría que recoger un estudio serio de la división de toda la caja única del sistema de seguridad social que sí existe

ilusión nacionalista precipitada desde luego eso es algo muy serio

que desde luego no se puede hacer de esta forma y respecto al partido

que sí que tiene reformas importantes que recoge la posibilidad de altas y bajas en las contingencias comunes que hasta ahora no se recogía

una diferencia muy clara y que va a permitir precisamente que transcurridos cinco días si los servicios médicos cuando la

no hayan contestado y es muy complicado contestar a todos los trabajadores en cinco días directamente se va a producir el alta de ese trabajador con lo cual si el alta no era correcta el trabajador ya va a recibir directamente el perjuicio y eso es una porque eso se va a producir así porque de facto es imposible poder hacer o atender a todos los trabajadores en el plazo que marca la reforma que ustedes han presentado y seguramente me va a decir cuando salga que ustedes que nosotros dejamos el fondo de pensiones sin nada porque siempre lo hacen cuando les llega el turno final

pero yo les voy a decir que los que sí dejan vacío el fondo de pensiones son ustedes porque nosotros en el año dos mil once lo dejamos con sesenta y seis mil ochocientos quince millónes de euros ustedes en el dos mil doce

en el dos mil trece a cincuenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro millónes

casi lo van a dejar sin nada con el consiguiente riesgo que esto supone para los trabajadores y además le añaden que encima le quitan dinero que le venía

mutuas y que ahora se va a quedar en sus reservar que va a dejar de ir al fondo de pensiones de la seguridad social con lo cual le vuelve a dar otra vuelta de tuerca para que le falte también aún más dinero a parte

un montón de dinero eskerrik asko entonces pues bueno me adelante porque lo dirá en la réplica y así se lo digo que no que son ustedes los que lo hacían eskerrik asko sánchez andrea eskerrik asko

bueno por empezar por el grupo socialista sí efectivamente aquel día fuimos

esta sala por hacer también otra reivindicación democrática y por eso

para ese día previsto debatirla aquí pues decayó y bueno pues no nos parece mal que debido a que efectivamente era una iniciativa

bueno que vamos a apoyar a favor de la iniciativa

porque creemos que recoge en gran medida los puntos que nosotros que nosotras proponíamos eajri

hitz egin dugu honetaz también ha mencionado la interpelación

en mayo creo que fue y también el señor darpón en aquella intervención decía lo voy a leer textualmente en lo que se refería a esta parte de la ley

esta parte de la ley que tal cual mente en lo que estamos debatiendo la parte

económica por incapacidad temporal derivada por contingencias comunes decía

afecta a las funciones que los sistemas de salud públicos llevamos a cabo en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes y no nos gusta

creo que dos o tres veces a lo largo de toda su intervención

en el congreso votasteis a favor de esta ley que salió también con los votos favorables del pnv

de rechazarla si es lo que realmente os parece porque cierto es

de vender ciertas bondades de la ley vuelvo a repetir que nosotros ninguna en ningún sentido y mucho menos en lo que se refiere a la salud de los trabajadores de las trabajadoras y a la salud en general de toda la sociedad además va a suponer como hemos dicho mucha más carga de trabajo para el personal de osakidetza también esta mañana a primera hora hemos

sobre la situación del personal de osakidetza pues aun más gracias a esta ley

una trabajadora o un trabajador enferma o enfermo cuando estuvieron compareciendo los cuatro sindicatos

de lab puso un ejemplo muy claro que voy a trasladar

y médicas pueden controlar a un trabajador o trabajadora estando de baja

que te da la baja segundo te manda a un especialista tercero

depende de qué sea lo que tengas la mutua te manda a otro especialista llevamos cuatro

entonces te cita la inspección médica después de hablar con tu medico de cabecera no está de acuerdo y no da el alta

te cita seis médicos para decidir sobre tu baja

qué tal estás o por tu salud y todo eso lo peor con dinero público

bueno no me voy a alargar mucho más yo creo que todos los grupos más o menos han trasladado la gran agresión

esta vez también contra un derecho fundamental que es el derecho a la salud que va a afectar no solamente a la clase trabajadora sino en general a la salud de toda la sociedad y

reiterar o pedirle al grupo de upyd y al resto también

tiene tiempo para rectificar que apoye esta iniciativa porque creo que es importante ese rechazo y además creo que no solamente el rechazo en el primer punto

pasos hacia delante para evitar que por lo menos con dinero público con recursos públicos se trate de privatizar la sanidad eskerrik asko zulaika andrea

en las réplicas creo que he explicado perfectamente cuáles son las razones

decía que no me hagan repetir continuamente los argumentos ya he explicado mis argumentos para

y creo que el camino más directo es derogar o cambiar la ley creo que esto es lo mejor que puede hacerse y es lo que está recogido en nuestra enmienda y creo que lo que el grupo socialista propone especialmente en punto tres es una especie

es una especie de nuevo sistema sanitario dual por un lado los vascos y por otro lado el resto de los ciudadanos españoles yo creo que este

es cambiar la ley por lo tanto tengan un poco de paciencia en cuanto gobiernen ustedes que va ser pronto cambian o

en fin todos seremos mucho más felices por lo tanto gracias por las insistencias pero me mantengo en la posición inicial votaría a favor de los primeros dos puntos

si no sale ninguno de ellos votaría a favor de mi enmienda les pido a todos que voten a favor de mi enmienda gracias eskerrik asko maneiro jauna

pedir realmente yo no sé de dónde se cae usted ahora no sé de dónde se cae porque si hay una cosa que la señora llanos ha dicho de nosotros precisamente y

que ha aprovechamos cualquier cosa para y no sé cómo era lo de pisuerga y todas estas cosas aprovechamos cualquier momento cualquier posibilidad

lo que consideramos justo esta mañana creo que esta cuestión ha sido bien desarrollada lo de pedir y conseguir por el señor joseba egibar sin más lo que yo le estoy diciendo

y se lo vuelvo a decir es que en el mundo real cuando vamos por el mundo real no vemos edificios volando vemos edificios que están cimentados en el mundo real

tampoco estas se hacen en el aire estas construcciones que es lo que usted nos propone necesitan un anclaje jurídico dónde propone anclar usted

esa es la cuestión dónde lo propone anclar yo le hago una propuesta de dónde

señora sánchez el señor itxaso el otro día ya nos dio

el señor maneiro parece que también está de acuerdo con ustedes o sea que van a ganar las elecciones el veinte de diciembre según lo que parece por el sondeo que se ha hecho aquí no sé si es un sondeo

yo lo único que le digo es que modifiquen esta normativa modifíquenla atendiendo al amplio consenso alrededor la ley veintisiete barra dos mil once modifíquenla no se olviden de modificarla

de paso que van a modificar esto cumplan otras normas por ejemplo cumplan la ley orgánica tres barra mil novecientos setenta y nueve la tres barra mil novecientos setenta y nueve también de paso la puede cumplir señora llanos

nos decían desde aquí siempre aprovechamos siempre los argumentos

lo que queremos nosotros como formación política lo que queremos en esta concreta cuestión es que se cumpla la ley y que no se enreden ustedes como se han enredado durante muchos años en marañas jurídicas ya hemos hablado de las marañas jurídicas la caja única esas marañas únicas al rededor la caja única no se enreden en marañas financieras vinculadas a la balanza y estas cuestiones ni en marañas buenistas esas marañas buenistas en la cual yo creo que usted

una experta el otro día nos dio un ejemplo estupendo de esto

ustedes quieren hacer el sexto curso sin haber aprobado tercero no algo así

que está al lado del dieciocho punto dos es la dieciocho punto uno la sanidad interior llevamos más de treinta años sacando

claro que si ustedes corrigen los exámenes ya sabemos lo que vamos a tener es decir

el buenismo no estamos hablando de esto estamos hablando de cumplir la ley
la ley que se pactó en mil novecientos setenta y nueve eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

sí muy brevemente a la señora sánchez

porque es que tampoco tenía contestación es decir porque en la primera intervención claro cuando uno abre turno

y son puros eslogan que detrás no tienen realidades y luego son contestadas pues claro evidentemente después no se pueden rebatir primero me ha hablado de que el alta la daba las mutuas

que es que el plazo era muy corto porque eran cinco días luego entonces la da el médico la da el médico pero es que el plazo es muy corto

el trabajador se merece que cuanto antes si hay una propuesta de alta se le conteste y cinco días pues habrá que tomar las medidas adecuadas para que esos cinco días sean

suficientes pero lo que no se puede decir es que porque solo son cinco días

y las mutuas deciden sobre el alta no es que no se puede mentir de esa manera porque luego la ley lo que está en la ley es lo que está en la ley y ahora ya no es que las mutuas daban el alta sino que es solo hay cinco días y no le iba a hablar

del fondo de pensiones

de verdad que el partido socialista me venga a hablar del saneamiento de las cuentas es que ya es que ya no merece comentarios es que no hay que sacar datos es que es

ustedes las cuentas de saneadas en cualquier ministerio y en cualquier administración

solo le voy a decir una cosa con las pensiones solo una cosa la diferencia es que ustedes la congelaron y nosotros se las hemos subido esa es la diferencia

se rompe uno de los mitos la recentralización

del gobierno de mariano rajoy que lo saca todo sin contar con nadie que como tiene mayoría absoluta pues no es más se valoró por parte de algún grupo parlamentario la disposición al diálogo que había tenido el gobierno en este asunto

prueba de ello es que es apoyado por más grupos

entre ellos el partido nacionalista vasco y usted me decía yo no me voy a enredar aquí con la caja única

ni con las balanzas porque mire se lo dije el otro día a una compañera suya no hay peor ciego que el que no quiere ver y yo le puedo decir aquí millónes de cosas pero si no admiten que hay un déficit en la seguridad social cuando eso es una resta pues a partir de ahí ya

no hay más que decir pero solo le voy a decir una cuestión usted dice que sacan ustedes sobresalientes y matrículas de honor mire si mi hijo se pusiese él mismo las notas cualquiera de los tres ya les digo yo ya le digo yo las notas que sacarían vamos todo sobresalientes

se lo corrigen los profesores y ya claro el sobresaliente y la matrícula de honor que el se había puesto

como mis hijos sobresalientes y matrículas de honor ya cuando